se trata pues de números para cubrir los derechos de las personas no de seleccionar algunas personas para que cuadren los números

en definitiva habla de eso de cómo este gobierno ha decidido suspender unas ayudas para que el presupuesto los números

de la misma temática que esta se ha hablado de la contención de gasto que obliga al presupuesto nosotros creemos que ese presupuesto permitía y permite mucho más de lo que se está haciendo creíamos y creemos

reconvino el otro día el portavoz parlamentario del partido nacionalista vasco no los diez mil seiscientos que decíamos con anterioridad

los quinientos ochenta millónes que planteaba y sigue planteando euskal herria bildu dentro de los cuales están treinta millónes más

se vea privada de una ayuda que probablemente le es necesaria pero sobre todo para que este parlamento para que este gobierno se ajuste a lo que dice que quiere defender porque este parlamento y en el punto anterior lo hemos vuelvo en el punto anterior a este sino en el anterior interpelación

temática que esta lo hemos vuelto a ver se preocupa por la falta de natalidad o por el descenso de la natalidad para ser más exacto se preocupa por el reparto del cuidado incluso

se preocupa por el envejecimiento activo de la población probablemente también se preocupe porque los jóvenes se tiene que ir fuera buscando lo que aquí no somos capaces de ofrecerles

cada vez más empobrecida y por tanto cada vez más susceptible de empeorar en sus condiciones de vida también las sanitarias

es que las ayudas se suspenden las ayudas a la conciliación se suspenden y lo que volvemos a ver es que en el presupuesto de este año lo que incluyen no va a ser suficiente

a lo de las nóminas en diferido que otros partidos pusieron en boga para cubrir determinadas vergüenzas

es que si este gobierno hace ya unos años de manera muy solemne y yo compartía esa posición proclamó la necesaria ley de igualdad

en esta comunidad autónoma y dentro de esa ley señalaba la necesidad de la conciliación del reparto del cuidado y la necesidad de estimular

lo que ustedes han decidido hacer con la suspensión de las ayudas es ir en la dirección contraria de esa ley de igualdad que fue calificada por ele entonces lehendakari

ibarretxe como el día más importante de su vida política no hemos sido nosotros quienes en todo caso han defraudado

para el lehendakari ibarretxe señalábamos en el texto en la justificación de la ley de la iniciativa que hemos presentado que su departamento ha interrumpido el pago de las ayudas correspondientes a las siguientes líneas alegando que no hay crédito suficiente

de trabajo para el cuidado de hijos e hijas esto que tiene que ver con la ley de igualdad de la que le he hablado

para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria aquí

de los grupos parlamentarios sobre la importancia de mantener el estado del bienestar el modelo social de esta comunidad incluso se ha llegado a decir

a este modelo social de bienestar y sin embargo lo que vemos con iniciativas concretas como estas es que ya no nos la adelgaza madrid ya no nos impone la troika las medidas que adelgazan que menguan que debilitan y que casi arruinan el estado de bienestar es que este gobierno funciona con esas lógicas

con otras partidas con las ayudas de emergencia social con la renta de garantía de ingresos con la escasa financiación a las haurreskolas son la escasa financiación a educación o sanidad con la no cobertura de plazas necesarias

lo vemos también cuando la apuesta por el empleo que debiera de ser un elemento fundamental

la tercera de las líneas de ayudas que cae en mala suerte por la congelación o por la interrupción del pago

también la realidad cuando planteábamos doscientos millónes de euros más desde euskal herria bildu para las políticas de empleo no lo hacíamos por engrosar la cantidad con una cifra más magra lo hacíamos precisamente para dar respuesta a todas estas necesidades

se nos habla de la necesidad de ser solidarios se nos habla de que este pueblo ha sabido acoger y ha sabido ser solidario para con otros y otras realidades pero lo que vemos a día de hoy es que cien mil personas y no son datos nuestros

una cifra que seguramente a todos nos preocupa y mucho y lo que vemos

que no se incrementan partidas necesarias en los presupuestos como las que he señalado hace un momento que en función de esa suspensión de ayudas les invitáramos a muchos ciudadanos no a todos a muchos ciudadanos y ciudadanas a que acudan al banco de alimentos para proveerse de lo que nosotros no pensamos darle aunque tengamos un presupuesto de diez mil ochocientos millónes donde perfectamente tendría que tener cabida

si realmente la prioridad son las personas y si lo prioritario lo fundamental es dar respuesta a sus necesidades y luego ya veremos de manera muy sencilla

lo que se gasta lo que se invierte en ayudas sociales en protección social efectiva entendida esta en su sentido más amplio no es un gasto es una inversión

nosotros lo que décimos es que se prioricen las inversiones que hay una jerarquía que determine qué es lo que es más importante y que por tanto en función de eso se invierta y nosotros lo hemos dicho con mucha claridad

las condiciones de vida digna para el conjunto de la población que invertir en cemento o que invertir en vías exploratorias sobre el fracking como se decía en un punto anterior porque sino lo que le estamos diciendo como decía a muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas es que o recurran a la caridad vía banco de alimentos u otras o que directamente y eso es

porque eso es a lo que les estamos abocando a lo que les están abocando con determinadas decisiones políticas porque esto sí es un recorte y yo lo voy a intentar explicar de manera muy clarita sé que todos lo entendemos ya pero si un ciudadano

y esa ayuda deja de percibirla durante unos meses durante todos esos meses él ha sufrido o ella ha sufrido un recorte sobre lo que percibía

si antes tenía esto y a esto le quitas esto tienen menos y eso es un recorte un recorte en sus condiciones de vida

la renta de garantía de ingresos y otros y en definitiva es un ejemplo el de las políticas de conciliación de una lectura global

papel que tiene que jugar este gobierno a la hora de corregir los desmanes de los mercados los desmanes de una crisis

la ciudadanía en general pero que está pagando de manera colectiva la ciudadanía en general y fundamentalmente los de abajo los que menos tienen se trata de invertir o de elegir en invertir en qué o en quién y nosotros preferimos invertir en quién en quién en las personas en el qué

cuando haya tiempo ya se debatirá cuando todas las necesidades sociales básicas estén cubiertas ya se verá hacia dónde porque como estamos de acuerdo en que es una inversión no entiendo

en lo que queremos que sea este país yo estoy convencido de que antes de esta interpelación

nos sigan separando muchas cosas a usted y a mí nos separe mucha distancia en torno a cuál es la visión sobre el modelo de sociedad o el modelo de país que queremos probablemente la misma distancia a la que le separa euskal herria bildu de los presupuestos sin embargo cogiendo una expresión del lehendakari en respuesta

decía que sin negociar no se puede llegar a acuerdos eso es lo que ha señalado el lehendakari urkullu bien

a estado siempre encima de la mesa la respuesta que hasta este día ha dado el gobierno del que usted formar parte es el silencio termino con una cuestión nosotros también creemos que como se dice allende el ebro que tienen que gobernar los mejores
y los mejores y gobernar para los mejores es gobernar para los que menos tienen porque nos están dando una lección de humildad eskerrik asko

quisiera reiterar que el agotamiento del crédito para las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar ha supuesto en la práctica un retraso mayor en la concesión de las ayudas al previsto una legislación que es de seis meses y no quiero minusvaloras esa situación

comparto que esa actuación ha generado un perjuicio en la situación de las familias que esperaban recibir esa ayuda en ese plazo de seis meses

que no es una desaparición y en ese sentido me alegro de que

de tanto repetirlo haya calado ya que usted no ha hablado en ningún momento de la desaparición y es algo que agradezco sí ha hablado de la suspensión o

la única comunidad en la que mantenemos este tipo de ayudas

debemos seguir manteniendo y profundizando en las mismas lo dije hace un mes y lo reitero comprendemos que muchas personas han tomado la decisión de solicitar una rebaja de su jornada laboral

en su puesto de trabajo para cuidar a sus hijos e hijas o a sus familiares dependientes y lo han hecho con la previsión de recibir

supone un perjuicio un trastorno pero en el peor de los casos seamos también conscientes que lo que va a ocurrir es que aumente el retraso actual en su cobro

saben con absoluta certeza que van a cobrar las ayudas que las van a cobrar en cuanto empecemos a ejecutar el presupuesto del dos mil quince en el mes de enero la partida en el proyecto de presupuestos para el año dos mil quince actualmente en tramitación prevé una cantidad

y es nuestra intención iniciar de la manera más urgente posible

si es que obtiene el apoyo de esta cámara el pago de estos atrasos generados en estos meses como he explicado con anterioridad en relación a visión que tiene este departamento sobre las políticas

creemos que las políticas de conciliación son extraordinariamente importantes pero también pensamos que es necesario hacer una reflexión en su conjunto

y en función de las diferentes necesidades y situaciones sociales y para el desarrollo de una adecuada política de conciliación

otras medidas que poco tienen que ver con unas ayudas económicas

que seguramente y a pesar del perjuicio no son la razón por la que las personas

solicitan las mismas muy en concreto en este apartado hay mucho recorrido en el ámbito del trabajo en el ámbito de las relaciones laborales aunque en estos momentos el clima por unas razones o por otras no parece desde luego el más favorable también quisiera recordar que lanbide

ayudas para que las empresas puedan llevar a cabo también políticas adecuadas para la conciliación de la vida laboral y familiar y de sus empleados y de sus empleadas lanbide dedica a este fin algo más de dos millónes de euros en el presupuesto del dos mil catorce y lo va a seguir haciendo en el presupuesto

presidente anderea yo he señalado la distancia que podían existir entre sus posiciones y las nuestras haciéndome eco

de un anterior debate el monográfico sobre pobreza donde lo que he hecho ha sido recoger una expresión equivalente que usted utilizó señalando la distancia o de parámetros la que nos movíamos pero vamos que en cualquier caso yo me alegro de que la distancia pueda no ser tal y en cualquier caso yo nunca he negado que determinadas cuestiones

puede no faltarle sensibilidad a la hora de acercarse a la materia lo que le falta es la ejecución en los hechos y precisamente de eso es lo que le queríamos hablar y de lo que no hemos hablado de las palabras y de los hechos

de su gobierno no se acompañan con los hechos y se quedan en buenas intenciones nosotros

recortar las distancias que recortar los derechos y por eso traíamos esta iniciativa hoy por eso hemos tenido una actitud muy clara con los presupuestos y por eso y se lo señalaba antes

es la del silencio la del mutismo absoluto por parte del gobierno del que usted forma parte

como garantizar la dignidad y los derechos al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país con independencia de cuál sea su nivel de renta y es que si no

cuadrar las cuentas parece que lo más importante es cuadrar las cuentas aunque esas cuentas esos diez mil ochocientos millónes de euros permitan los treinta millónes de conciliación

o más millónes que pudiera plantear cualquier otra formación política porque en diez mil ochocientos millónes de euros

pertsonak helburu no tendría que haber ningún problema para

presupuestariamente todas las necesidades y para garantizar todas las necesidades sociales de las personas y eso no se hace no se hace con las ayudas de conciliación y no se hace con el conjunto de los presupuestos y usted nos señala lo de los derechos subjetivos probablemente este sea otro debate pero

cuando habla de una parte pero una buena parte de la ciudadanía al menos no entiende que la rgi como derecho subjetivo tenga que ser obligatorio lo entiende bien

aes que obedecen a una situación de emergencia en la que uno puede o no puede hacer frente pues no lo sea es decir que todo

que en cualquier caso se puede tener pero la realidad es que incluso con los derechos subjetivos hay dificultades porque con la rgi que usted dice que como la propia ley establece estamos obligados a proveer pues nos encontramos con que por un endurecimiento de las condiciones de acceso y por

y no la perciben y durante dieciocho meses pues nuevamente o bien de la caridad y del asistencialismo de sus vecinos si tienen suerte o comen piedras y eso pasó hace dos días en barakaldo

había pedido la renta de garantía de ingresos cumpliendo todos los requisitos señalando al ararteko incluso a lanbide que cumplía todos los requisitos pero

le iba denegando porque expiraban los plazos por uno o dos días

ni siquiera los derechos subjetivos somos capaces de pasar de las palabras a los hechos y yo no he hablado de desaparición y es cierto y no tengo ningún problema en decir que lo he hecho de manera muy consciente pero es que el problema que se nos plantea es otro si usted

y no es descabellado pensar que en julio se vuelvan a interrumpir las ayudas porque teniendo que cubrir las del año anterior más lo que corresponda de enero a julio vuelva a quedarse sin dinero esa es la realidad y nosotros nos limitamos a señalar una cuestión este parlamento ya se expresó de forma mayoritaria sobre lo que quería que hiciera este gobierno y este gobierno ha decidido no hacerlo así de sencillo

que quería que se cubrieran las ayudas de conciliación y usted

es así termino con una cuestión

como una necesaria acción para garantizar los derechos de todos y todas para que en definitiva sea el gobierno de y para los mejores porque como le decía antes los mejores
son la gente que con todo lo que están sufriendo todavía hoy siguen creyendo en la democracia y siguen creyendo en el estado del bienestar eskerrik asko matute jauna aburto jauna zurea da hitza

requiere pasar de las palabras a los hechos es evidente si nos quedáramos solo en palabras serían palabras huecas baldías y sin ninguna acción de gobierno no le parece que subir la cantidad de diecisiete a treinta millónes de alguna manera

pero de alguna manera es pasar de las palabras a los hechos a mí me parece que sí me parece que es un paso me parece que es un paso importante

se nos dice también y ahí en esta segunda ocasión igual que en la primera se le ha deslizado también otra vez la expresión

no hemos recortado derechos en este caso con las ayudas a la conciliación no lo hemos hecho sería bueno también que seamos capaces de trasladar a la ciudadanía las expresiones de la manera más objetiva posible les hemos generado un perjuicio no tengo ninguna duda y en eso estamos de acuerdo pero no hemos recortado ningún derecho

no existe tal derecho fundamentalmente usted aprobó seguramente en esta cámara

y sabe casi mejor que yo que no estamos hablando de un derecho

no cabe duda que es un objetivo del gobierno no del gobierno es un objetivo de todo gobierno es un objetivo de toda institución

no queda otro remedio y además con una peculiaridad que en este país por unanimidad hemos decidido cuáles son los ingresos de los que disponemos

y luego hacemos el reparto de esos ingresos por lo tanto no queda otro remedio que cuadrar las cuentas con esos ingresos que vamos a tener

como el guadiana que aparece y desaparece no puede ser que para unos sea un coladero y que para otros

luego seguramente alguien no está diciendo toda la verdad

ha hecho serios esfuerzos que el ararteko ha reconocido que lanbide funciona adecuadamente para que las peticiones

se solventen en el plazo legalmente establecido yo creo que eso está hoy día ya reconocido y sería bueno reconocerlo también y yo lo quiero hacer públicamente por reconocer el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de lanbide se ha dicho también que este gobierno

que no lo iba a cubrir no este gobierno no decidió eso este gobierno decidió que no lo podía cubrir en ese momento y que lo va a cubrir en el mes de enero

esas ayudas que lasva a cobrar con retraso pero que las va a cobrar y se dice también que no van a llegar yo no sé si van a llegar o no van a llegar

en curso hemos pagado casi cerca de los nueve meses ocho meses y pico seis meses del año anterior dos meses y pico eso quiere decir

prácticamente dieciséis meses eso quiere decir que debiéramos ser capaces de cumplir la ley nuevamente en este año dos mil quince y ver cómo evoluciona yo no me atrevo a decir que no vaya a llegar

lo que quiero decir es que se ha hecho un esfuerzo muy importante que se van a poder pagar todas y cada una de las ayudas y que se va a mantener el decreto

en el presupuesto del año dos mil quince otras partidas importantes que tienen que ver con otros derechos subjetivos se han presupuestado seguramente de una manera mucho más

pudieran generarse excedentes que este año han tenido que ir a la eenta de garantía de ingresos y que el año que viene quizá

en el caso de que hubiera esa necesidad en este ámbito

señora consejera ya le han preguntado antes sobre esta misma cuestión la noticia se desata hace un mes cuando la autoridad vasca de la competencia anuncia que abre expediente

adjudicatarias del servicio de catering para los comedores escolares adjudicación que cada año realiza el departamento de educación y abre expediente por haberse repartido

fraudulenta la denuncia parte de una empresa del sector aibak la autoridad vasca de la competencia dice que hay serios indicios de prácticas

en los precios de esos hechos podría deducirse que las empresas habrían pactado un mecanismo de presentación de ofertas acordado previamente para repartirse el mercado lo que les habría llevado a obtener precios más altos y por lo tanto se habría producido un perjuicio para la administración

y también lógicamente para los ciudadanos que habrían pagado estarían pagando más por

la empresa denunciante ha asegurado que los precios que ofertaban las adjudicatarias eran un treinta por ciento superior a los que se están pagando en los colegios de la red concertada y en los privados por el mismo servicio lo que representaría unos doscientos millónes de euros de sobrecoste de la última década por tanto yo le pregunto si considera que el departamento de educación

si han sido lo suficientemente vigilantes para garantizar que los concursos de prestación del servicio de comedores escolares

mahaiburu andrea maneiro jauna tal y como usted ha mencionado la autoridad vasca de la competencia

con comedores de gestión directa dependientes del departamento el pasado ocho de agosto

como es sabido la autoridad vasca de la competencia tiene encomendado por su ley de creación la ley uno barra dos mil doce como ya he mencionado en

la finalidad de promover garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado

a fin de que la autoridad vasca de la competencia pueda desarrollar su cometido
sin que quepa hacer valoraciones o trasladar datos que forman parte de dicho procedimiento eskerrik asko

silencio parlamentario por parte de la consejera de educación en fin veremos cómo acaba este asunto pero yo le hacía una pregunta muy concreta si

si el departamento considera que este departamento y los departamentos anteriores han actuado de manera diligente qué es lo que usted tiene que decir al respecto digamos por favor algo ya digo veremos cómo acaba pero todo resulta bastante sospechoso por lo tanto yo le pregunto qué es lo que ha ocurrido aquí durante los últimos años qué sospechas usted tiene o qué es exactamente lo que sabe

anticompetitivas estamos hablando presuntamente quizás de doscientos millónes de euros de pérdidas para la administración y por lo tanto para los ciudadanos por lo tanto yo le pregunto de nuevo si el departamento de educación

durante la última década si sospechaba que se estaban produciendo prácticas concertadas de precios y de reparto del mercado si usted sabe algo o si no lo sabe si nunca le resultó sospechoso que fueran siempre las mismas empresas las que se llevaban los contratos y además los mismos lotes en fin usted y los gobiernos anteriores si no le extrañó que los precios fueran tan qué opinión le merece a usted este asunto queremos conocer su opinión más allá de saber también efectivamente qué es lo que va a hacer el departamento a partir de ahora ya digo que el asunto tiene muy mala pinta y conviene aclararlo cuanto antes

valoraciones información si sé si sospecho ya le he dicho que no puedo contestar ya se lo he dicho en la primera parte mientras esté el expediente abierto no podemos

este departamento adopta todas sus decisiones con pleno sometimiento al principio de legalidad aplicable a todas las administraciones públicas esto es con absoluto respeto a la legislación vigente y en concreto en el ámbito que nos ocupa al texto refundido de la ley de contratos del sector público y demás normativa aplicable por razón de la materia como es sabido dicha normativa proclama como a principios inspiradores de la contratación administrativa la publicidad concurrencia y objetividad
y como no podía ser de otro modo la actuación del gobierno en materia de contratación se ajusta a dichos principios eskerrik asko uriarte

sintonizatzen cada vasco y cada vasca aporta euros anuales para financiar un servicio público que solo utiliza una minoría y esta cada día es menor biztanleko

no está respondiendo a los principios y objetivos para los que nació de la vulneración de algunos de esos principios hemos venido hablando en varias ocasiones tanto en pleno como en comisión en esta cámara hoy queremos hablar del objetivo del fomento y desarrollo del euskera

en su mandato los programas que emite e te be uno tienen audiencias ínfimas y cada día son menores y no es de extrañar teniendo en cuenta la oferta que se programa algo que no funciona habitualmente

cómo es posible que la cadena que debe favorecer el euskera emita horas y horas seguidas de un programa mudo como kamara ezkutua continúe con conciertos de

y se justifique solo con algo de deporte y dos ediciones diarias del gaur egun por eso a pesar de las declaraciones de intenciones y de proclamar

sigue sin atraer a los euskaldunes como responsable en el gobierno tanto de e i te be

qué medidas piensa adoptar para cumplir los objetivos que aparecen en la ley de creación del ente público radio televisión vasca en su artículo tres apartado h referido a la promoción

una de las ocho líneas estratégicas recogidas en el plan estratégico dos mil trece dos mil dieciséis consiste precisamente en reforzar la audiencia en euskera para afianzar el prestigio social

esto significa generar un espacio de comunicación vasco con una oferta atractiva que logre conectar con nuevos públicos

en todos los soportes e i te be está trabajando para buscar activamente el encuentro con la audiencia euskaldun para consolidar una oferta variada de actualidad divulgación y entretenimiento en euskera

se ha adquirido el compromiso de ofrecer diariamente diez horas de contenido nuevo en e te be uno para lograr particularmente

también diariamente una tira de producción propia para la audiencia infantil de etb hiru para generar un espacio infantil propio y referente por tanto señor unzalu

proyectos y proyectos pero usted no me responde no me dice qué pasa cuando

vascos euskaldunes vascas euskaldunes que ven euskera que a primeros de año usted no me contesta por qué las audiencias rara vez suben del dos por ciento por qué se mantienen intactas en torno del uno coma cinco por ciento no me está respondiendo a lo que yo le pregunto por qué

e te be uno concretamente cada día tiene peores audiencias

cuando le he dicho las programaciones que ustedes han hecho me está diciendo que van a hacer diez horas de euskera y qué pasa con kamara ezkutua

cuántas horas ha tenido kamara ezkutua en este verano mire usted lo que ocurre es que

pero cada vez hay menos euskaldunes que ven e te be uno ese es su problema y eso es

en un país donde los menores de treinta y cinco años conocen son capaces de entender el euskera no sintonizan e te be uno qué es lo que pasa que están haciendo una programación adecuada a ellos o es que están haciendo una programación que no tiene nada que ver con los intereses de esa población euskaldun eso es lo que le estoy preguntado y usted me dice proyectos proyectos

qué está pasando por qué por qué no se consigue que esos jóvenes

no sintonizan por qué la población euskaldun huye de e te be uno no hay más que una razón no programan ustedes adecuadamente a los

señora presidenta señoras y señores parlamentarios señores y señoras consejeras bien

ha empeorado y han sido muchas las voces que fundamentalmente a lo largo de este año han reclamado una mejor

una mayor seguridad fundamentalmente en el ámbito rural en las explotaciones y zonas rurales del territorio histórico de álava ahí están sindicatos policiales

agricultores alcaldes y responsables municipales asociaciones de vecinos

la verdad para reforzar la seguridad para mejorar los tiempos de respuesta para aumentar la presencia policial para facilitar procedimientos y para facilitar

con robos y con desperfectos en explotaciones causados por delincuentes

el uno y el dos de octubre que el departamento había hecho público un plan

para álava en el que según se decía revisa reordena las demarcaciones

las tres comisarias de las tres ertzain etxeas de álava para con el fin supuestamente de reforzar la seguridad

sesiones se sustanció una interpelación y un moción

rurales especialmente en álava por aquel entonces alcaldes de municipios alaveses y responsables municipales solicitaron al departamento de seguridad del gobierno vasco el aumento de la presencia de la ertzaintza

oleada de robos registradas en los últimos meses en viviendas

medidas para la prevención de robos en zonas agrícolas y solicitaban también en aquella época un plan para evitar este tipo de delincuencia que según decían proliferaban en determinados puntos vulnerables en determinadas épocas y con una características que ya se ha valorado y que son como especiales en relación con las zonas

rurales apartadas es decir en la provincia de álava que es como todos sabemos la más extensa también en aquel momento y hace poco porque era en el anterior periodo de sesiones es decir a principios

realizaban propuestas concretas indicaban especiales situaciones afectadas por un posible déficit de control policial

profesionales y eso ha quedado de manifiesto y ahí están las declaraciones las notas de prensa las páginas webs y

diferentes ámbitos señora consejera desde entonces

robos y actuaciones contra zonas rurales explotaciones pabellones agrícolas y en el momento actual

representantes municipales por agricultores en las zonas rurales y por determinados sindicatos de la ertzaintza se suman las denuncias que

de álava que han manifestado y manifestó lo vimos todos

su preocupación por el aumento de robos en los terrenos de cultivo en álava

los asaltos y bueno desde luego en esa declaración

profesional de agricultores y ganaderos de álava exigía

los sindicatos policiales o representantes municipales

asociaciones de vecinos etcétera en aquella época el departamento de interior y su titular

hicieron caso omiso a aquellos requerimientos que se plantearon y desde este grupo parlamentario por ello en el anterior periodo de sesiones

ante las denuncias presentadas pero ya va siendo hora de que se aborde por parte de los responsables de la policía autónoma un auténtico plan de actuación que incremente y mejore la presencia policial y la investigación y resolución de

en la zona rural de momento a través de una iniciativa

que vimos en prensa a principios de octubre hemos visto que esta reordenación se puede decir que no es un plan

nosotros en definitiva queremos saber conocer los objetivos

por lo visto se trata de un documento que pone de relieve que no solo se reduce el número de agentes en álava sino que se producen

duplicidades no aclaradas ya que se forma a los agentes en trabajos que ya realizan otras instituciones como la diputación foral de álava como cuestiones vinculadas a caza pesca medio ambiente

qué es lo que plantea el documento sobre la restructuración

de esa información es estadística sobre la población de álava y a partir de esos datos sin que se explique ningún análisis se anuncia una modificación de demarcaciones

no se justifica a qué obedece qué estudios

de reacción de respuesta a las patrullas es decir ese documento no hay nada que podríamos estar ante un cambio

cosmética y además incluso con posibles errores

información es un documento que no es un plan y en ese sentido

uno de los datos sin aclarar es que la comisaria de llodio pasa a encargarse también de localidades vizcaínas como arakaldo y

será todo lo que supone en la práctica es que se van a detraer recursos de esos pocos que hay en álava

necesidades de bizkaia ya atendíamos también a

ahí está se aumenta todavía la presencia de las demarcaciones la presencia policial alavesa hacia otros territorios por su parte

se produce una modificación real de la plantilla con menos agentes sin que ello tenga una repercusión en las comisarias

el número de agentes y además que algunos ertzainas trabajando para la demarcación

hay cuestiones en este documento sin explicar

solicitud esta interpelación qué criterios

ha abordado el gobierno vasco la reorganización de la seguridad en las zonas rurales del territorio histórico de álava pues sabiendo y viendo que en esa seguridad

protección fundamentalmente las zonas agrícolas y rurales
pues estamos caminando hacia atrás pues usted señora beltrán de heredia nos lo explicará eskerrik asko barrio jauna

señor barrio hay una cuestión previa que no quiero dejar pasar por alto es una cuestión que usted expresaba en su escrito y que ahora lo ha repetido verbalmente una cuestión que no puedo pasar por alto ahora que me pide hablar del plan de seguridad en álava habla usted en su escrito y lo ha dicho nuevamente

de asaltos habla de asaltos y que se han producido medio centenar de asaltos dice que uaga ha contabilizado medio centenar de asaltos lo dice y lo pone

de oír pero no aporta ni el más mínimo detalle de lo que tenemos que entender por asalto asalto

asaltos a qué asaltos dónde asaltos cuándo

no es la primera vez que usted utiliza expresiones alarmantes de este tipo expresiones para hablar de la seguridad de araba lo hizo

habló de oleada de robos ahora habla de asaltos la próxima vez de qué va a hablar de hecatombe en la seguridad de araba y lo va a hacer con un único

un titular que no refleja para nada la realidad y usted lo sabe bien porque dispone de los datos que le hemos facilitado la percepción de seguridad se lo dije y le repito es un tema suficientemente delicado como para que utilicemos determinadas expresiones y conceptos bien a la ligera conceptos

pero que si no se ajustan a la realidad además generan una alarma innecesaria contribuyen a generar

porque la realidad le repito y usted lo sabe es muy distinta y los datos objetivos no dan motivos para alarmar por tanto le pido que no lo haga y por eso quiero reprocharle esta actitud hace quince días apenas ha tenido acceso a los datos de la reorganización de la seguridad en álava datos de las modificaciones que estamos implantando en la organización de la seguridad en este territorio datos recogidos en el documento que usted solicitó y documento en el que se plasma la información detallada de las denuncias que se han recogido por la ertzaintza hasta septiembre de este año

pero usted habla de medio centenar de asaltos y eso es una barbaridad por suerte no vivimos en la ley de la selva álava no es una selva los parámetros de seguridad en álava y también en las zonas rurales no dan motivo para expresiones como las que usted

en cualquier caso le reconozco siempre hay problemas de seguridad que solucionar el tema de los robos sean en el medio rural sean en la ciudad es uno de los problemas a los que tenemos que responder y que tenemos que atajar y en este sentido el documento

al grupo popular sobre el plan de seguridad se detallan los aspectos nucleares de este cambio son cambios que han venido a reorganizar a redimensionar y a reforzar la seguridad en álava

por una parte se ha hecho una reorganización de las demarcaciones de las comisarías de laudio

buscando efectividad porque es que da la casualidad

de las comisarías no corresponden con los límites de los territorios porque lo que estamos es para prestar un servicio a toda la comunidad

para álava y dedicados exclusivamente a álava a bizkaia o a gipuzkoa nuestra responsabilidad es todo

en concreto las modificaciones que se han producido usted ha comentado aquí algunas es que a la comisaría de laudio efectivamente se han incorporado los municipios de arakaldo y arrankudiaga y se ha sacado de esa demarcación la zona de gaubea valdegovía

a la demarcación de vitoria gasteiz un cambio operativo lógico habida cuenta también del desarrollo que durante todos estos años ha tenido la red viaria con este cambio lo que se persigue es mejorar los servicios de patrullaje evitar tiempos de traslado no operativos y agilizar los tiempos de respuesta por su parte la comisaría de laguardia ha asumido la comarca de montaña alavesa que antes en parte

consecuencia de estos cambios también se ha producido una reasignación de los efectivos por comisaría y ha utilizado usted un dato falso también cuando dice que hay menos ertzainas mire en álava

había más ertzainas más efectivos que en noviembre de dos mil doce

hay más efectivos que en noviembre de dos mil trece pero además quiero hacerle hincapié en otro

de álava y en el resto de los territorios además de los servicios de los que dispone cada una de las comisarías hay otra serie de servicios territoriales de investigación

refuerzan esta seguridad todas las comisarías tanto en este territorio como en otros cuentan con el apoyo de las unidades

es necesario en total estamos hablando de más

repito más de mil de agentes agentes de seguridad ciudadana agentes de investigación

agentes de investigación territorial y también el servicio de miñones en cualquier caso son cifras que nos hablan de una media

trescientos veinticinco habitantes a todo esto tenemos que sumar también las policías locales

colaboración con la policía local de gasteiz también con la de laudio y con la de amurrio coordinación y colaboración que se está haciendo extensiva

vigilancia y control de tráfico en las tareas de seguridad vial en las tareas de vigilancia de las pruebas deportivas y también en los planes de vialidad

pero también quiero subrayar que estamos precisamente ahora hablando con los sindicatos en la modificación de la nueva rpt de la nueva relación de puestos de trabajo y presumiblemente a final de dos mil quince también tendremos

la reorganización de la seguridad en álava también responde a una tercera cuestión

de las correspondientes acciones formativas para un mejor conocimiento de la problemática rural de su evolución y de sus peculiaridades peculiaridades y especificidades que presenta desde el punto de vista de la seguridad se trata de planes especiales para hacer frente a circunstancias específicas planes que incidirán especialmente en los riesgos

a determinadas labores agrícolas como la época de riegos o como la época de recolección

y esto son fruto de los encuentros que hemos mantenido tanto con los representantes

municipales encuentros de los que usted tiene razón de ellos porque también representantes municipales de su partido

encuentros que se han mantenido con las propias unidades de las comisarías de referencia y que han servido para establecer vías de comunicación directas directas entre los responsables policiales entre los representantes municipales y también entre los representantes del sindicato agrario y ganadero de álava vías como digo para que faciliten un conocimiento mutuo para que faciliten una cercanía

faciliten la proximidad y en este período concreto desde la presentación del plan en septiembre hasta hoy

vendimia que se ha producido y que se ha cerrado con tranquilidad el número de delitos y faltas en álava ha bajado

la comparativa con el ejercicio dos mil trece quinientos dos denuncias menos quinientos dos denuncias menos señor barrio y esto

reales treinta y dos coma siete delitos y faltas

a los treinta y nueve coma ochenta y seis con los que cerramos el año pasado bien es cierto que a falta de cerrar estos dos meses pero estos son los datos reales

por lo cual no encuentro sentido a esas palabras alarmantes que vienen por su parte eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea barrio jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta gracias

complicado y la verdad es que yo no sé en qué realidad vive no son palabras alarmantes

veo me dicen analizo percibe la ciudadanía y es lo que yo hago y no buscar titulares de periódicos y en este tema mucho menos que en cualquier otro mire yo llevo

de ver de controlar la acción del gobierno tratar de impulsarla si se me ocurre algo interesante y entender que

tenemos un problema señora beltrán de heredia y yo usted me atribuye palabras o titulares

no es terminología además no es una cuestión de terminología asaltos pues no

pero usted señora beltrán de heredia usted tiene que entrar en materia

un documento que no es ni con mucho un plan que necesita objetivos que necesita estrategia y que necesita medidas y que no tiene nada

acierte en que haya que coordinar los esfuerzos de la ertzaintza con las policías locales o con los miñones es que primero los miñones son una sección de la ertzaintza y lo segundo las policías locales que dice la ley que tiene que

lo demás sería seguir incrementando en los desaciertos pero yo señora

es que ahí está lo que percibe la ciudadanía no es decir

con álava con ochenta y siete agentes menos eso es lo que percibe la ciudadanía equipos mixtos de inspectores oculares ante la falta de especialistas

la situación de la policía autonómica en álava y alertan de la falta de efectivos de medios y de organización no lo dice el partido popular señora

seguridad ciudadana trabajamos para la estadística oficial dicen y eso es una entrevista un contacto de quince

que todos los vitorianos y todos los alaveses pudieron leer no

pantalón desde hace meses un relevo de efectivos más que traumático es decir ahí esta y yo me tengo que hacer eco de esas cuestiones y usted le tiene que dar respuesta a todas estas cuestiones usted me dice que yo hablo de asaltos mire los agricultores exigen más vigilancia para frenar robos

en parcelas y pide a la ertzaintza que refuerce la presencia de patrullas eso me lo he inventado yo

ha contestado usted a los comunicados eso es lo que nos tiene que explicar haber qué a dicho haber cómo han tratado este tema

o montaña alavesa y se dan una serie de datos no seré yo quien se esté

un repunte de robos la federación de vecinos se suma a las peticiones para que seguridad abra dos comisarías más en álava también lo hace

en datos oficiales del ministerio las sustracciones

agrícolas y ganaderas en el primer trimestre de dos mil trece

primer trimestre de dos mil catorce veintiséis por ciento más es que son datos objetivos que están ahí

y además ahora tenemos que decir y recordar una cuestión que es definitiva bizkaia once comisarías

gipuzkoa once comisarías de la ertzaintza álava el territorio más extenso

la provincia más grande de las tres tres comisarías de la ertzaintza con una cerrada salvatierra y los sindicatos

reorganización en ese sentido abrir porque las actuales

veintitrés laguardia veintidós vitoria nueve llodio con dos vizcaínas además ese es el elemento fundamental y además
sí que hay menos porque en la nueva rpt va a haber menos eskerrik asko barrio jauna

estamos en euskadi está usted utilizando datos falsos mire delitos y faltas en álava han bajado estoy dando datos de

han bajado un cuatro coma sesenta y cuatro por ciento robos con violencia esos asaltos de los que usted habla han bajado un diecinueve coma seis por ciento estos son los datos reales señor barrio

y este plan de organización de la seguridad en araba no es una isla

adaptar a la ertzaintza a este tiempo y para construir su futuro

que llevan a integrarnos mejor en el conjunto de actores

de seguridad pública de euskadi y en concreto el plan que hemos gestionado durante estos dos últimos meses en álava ha venido acompañado de actuaciones concretas se lo voy a decir el primero de ellos y lo he citado antes de datos de delitos y faltas está bajando de enero a octubre hemos bajado un cuatro coma sesenta y cuatro por ciento respecto al mismo período en el ejercicio anterior

hemos activado patrullas especiales de vigilancia nocturna

otras unidades para no afectar el normal funcionamiento de las comisarias

fruto de estos planes específicos fruto de las labores de investigación que se han estado llevando a cabo el pasado diez de octubre se desactivó

en la ejecución de este tipo de robos que afectaban fundamentalmente a gasteiz la semana pasada se detuvieron

con robos de material agrícola en rioja alavesa

en gasteiz fundamentalmente en relación con elementos peligrosos también atendiendo a una demanda y a una preocupación por parte de los representantes del sindicato agrario y ganadero y esta es la realidad y vuelvo a insistirle

que nada tienen que ver con la realidad insisto álava

vestidos de arriba a abajo con cabeza y con pies andando por la calle con uno o dos pantalones para cambiarse

reales tiene más y esta es la realidad señor carmelo barrio

explicarle que la gestión de la seguridad pública además es algo dinámico y cambiante y por tanto tenemos que estar adaptados de nada sirve creo crear esos

imaginar situaciones de inseguridad que no son las reales y que no se corresponden para nada con la realidad le insisto más

más agentes en araba que los que había en dos mil trece y respecto a esa presunta disminución que plantea la rpt le he dicho se está negociando con los sindicatos una plaza

y usted sabe perfectamente de qué le estoy hablando eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua

es evidente que los controles policiales pueden producir molestias a los ciudadanos en determinadas ocasiones pero no es menos evidente que son necesarios no para completar un anuario estadístico ese que ha usted tanto le importa y que en muchas ocasiones maquilla sino

luchar de forma más eficaz contra los distintos tipos de delito por ello nosotros defendemos la necesidad de que se realicen controles policiales porque más allá de las molestias como digo que puedan ocasionar la lucha contra el delito en cualquiera de sus variantes debe ser una prioridad para cualquier responsable público

no forman parte de las quejas preferentes ni fundamentales que tienen los ciudadanos a lo largo de mi vida política no he visto ni un solo barómetro sociológico donde la supresión de los controles policiales

sí es una prioridad una buena gestión de la seguridad pública sí es una prioridad que

por lo tanto estamos ante una cuestión más política que ciudadana y que usted

en función del color del uniforme policial que realiza los controles y lo décimos porque usted textualmente dijo en una radio existe un enfado entre la ciudadanía vasca a causa de los controles

del artículo que se publicó en gara de las llamadas que se produjeron en gara de las palabras del señor errekondo por el contrario muchos sindicatos dicen

un control por cada uno de los turnos ante este hecho contradictorio le quiero preguntar por qué son molestos los controles si los realiza la guardia civil y en cambio son necesarios cuando los realiza la ertzaintza

controles de seguridad generan algún tipo de molestia claro es evidente

en orden también nos molesta insisto señora llanos los controles de seguridad nos generan siempre alguna molestia por pequeña que sea siempre generan alguna molestia pero se trata de controles de seguridad y de mecanismos que sirven para gestionar y garantizar nuestra seguridad y es normal que los ciudadanos y ciudadanas aceptemos de algún grado

sean de la guardia civil sean de la policía nacional o sean

en cualquier caso la diferencia estará en primer lugar

y cómo no también en la manera en se efectúen estos controles en la intensidad de los mismos

en definitiva en la correlación entre los objetivos de seguridad logrados y la frecuencia e intensidad con la que afecte el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos

procura siempre no generar molestias y cuando las genera recibe las quejas de los ciudadanos y las ciudadanas y atendemos esas quejas y nos llegan las quejas

llegan las quejas y las preocupaciones por los controles que realizan otras fuerzas de seguridad nosotros atendemos y respondemos de los controles que nosotros realizamos

las correspondientes explicaciones respecto a nuestros controles pero no podemos explicar los controles que realizan las fuerzas de seguridad del estado eskerrik asko eskerrik asko

explicar pero sí nos puede censurar porque le repito usted los califica de molestos

se les hace el control por la mañana cuando salen de su caso y por la tarde cuando vuelven y eso dicho por los propios agentes de la ertzaintza es que usted tiene una doble vara de medir

a decirlo con eso tan del gusto de los nacionalistas que es el alde hemendik el que se vayan el que se vayan ese es el fondo de la cuestión

no se atreve a decirlo usted lo que quiere es que

aquí en euskadi y desde luego esta forma de actuar viene siendo ya un clásico en el devenir

le viene muy bien para maquillar y para tapar su propia ineptitud en la gestión de la ertzaintza

que consiguió que todos que todos los sindicatos protestaran por el plan estratégico horizonte dos mil dieciséis que todos censurasen la gestión y la organización

atesora ese merito comisarias con falta de personal ciudadanos desatendidos quejas que no se pueden poner porque se presionan a los ciudadanos para que no pongan las quejas serán las únicas que se reciben las de los controles de la guardia civil escasez de patrullas

ese es el sello político y el sello de su gestión política

que habían disminuido los robos en casa habitada y le tengo que decir que en cambio en el informe de la fiscalía decían que había subido y sabe por qué sabe por qué hay esa disparidad porque se obliga a introducir como delito de daños lo que es un delito de robos para qué las estadísticas y nosotros por lo que apostamos es por la colaboración y por la coordinación entre las fuerzas los ciudadanos lo que nos reclaman es que no nos perdamos en esto sino que les demos una buena un servicio policial y ese usted no se lo está dando

señora llanos volviendo al tema que nos ha traído aquí porque quien ha tratado de desviar la atención ha sido usted con otras cuestiones hemos venido a hablar de los controles

miles de controles efectivamente gracias a ellos tenemos los niveles de seguridad que tenemos gracias a ellos tenemos la

como país más seguro diez sobre diez y también tiene que saber

hemos realizado diez controles de los denominados paliativos

huyendo de la policía o bien controlar eventos de alto riesgo se trata de controles más intensivos donde participan al menos tres patrullas y de eso estamos hablando

que determinados controles de la guardia civil y de la policía nacional tal y como se están efectuando tal y como se están realizando

no tienen justificación suficiente desde el punto de vista de la seguridad operativa que presuntamente fórmulas viejas para realidades nuevas señora llanos prácticas caducas para las necesidades de seguridad actuales herramientas que tuvieron su utilidad en otros tiempos pero que chirrían en el manejo de realidades nuevas no es la primera vez que lo décimos y no es únicamente en este foro que lo décimos se podrán seguir argumentando que son necesarios que tienen objetivos claros podrá usted argumentar incluso nuestra pero esa no es la realidad con ello no vamos a evitar que haya personas que están afectadas y que se sientan molestas y por tanto que ejerzan también su derecho a expresar ese malestar y esa ciudadanos y ciudadanas que hay que atender y es evidente que desconocemos la respuesta que deberían recibir por ejemplo los ciudadanos que ayer

sí gracias señora consejera usted se lo acaban de decir

no entender los controles de la guardia civil usted dijo esto en una entrevista radiofónica que por cierto espero que no pagada por el gobierno vasco

en una entrevista radiofónica dijo que los controles de la guardia civil no están justificados y que provocan muchas molestias a la ciudadanía y usted diciendo esto ha puesto en duda y atacado la profesionalidad de la guardia civil y lo ha hecho de manera irresponsable y absolutamente gratuita

con el objetivo de desprestigiar a la guardia civil para poner en duda su trabajo porque ese ha sido su último objetivo hacer propaganda y fomentar la teoría del que se vayan esto es lo que usted ha pretendido hacer en esa entrevista radiofónica usted no ha pretendido resolver un problema

propaganda propaganda barata en todo caso díganos por qué considera injustificados

la guardia civil en euskadi considera que no son necesarios considera señora consejera que es serio actuar de este modo decir estas cosas en una entrevista radiofónica señora consejera usted es consejera usted no habla con el ministro no tiene su teléfono

por qué actúa de esa manera tan irresponsable gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eskerrik asko señor maneiro poco me queda que añadir a lo que

anteriormente por qué considero injustificados algunos de los controles de la guardia civil y de la policía nacional lo he explicado antes y

principalmente realiza la guardia civil en distintos puntos de las autopistas de euskadi se trata de controles de tipo paliativo

creo que haga falta que me extienda aquí en las características que tienen estos controles son suficientemente habituales

como para que todos y todas tengamos una idea grafica del tipo de controles de los que estamos hablando en cualquier caso si no ha tenido usted ocasión

de coincidir con algunos de ellos recientemente le invito a realizar una

simplemente con los parámetros controles de la guardia civil en euskadi o controles de la guardia civil en españa

la diferencia entre los controles que se realizan aquí el tipo de controles y los controles que se realizan en el resto del estado

controles ha realizado la guardia civil comunicados a la

muchos de ellos en autopistas en zonas de peaje en zonas de tránsito en vías rápidas de tránsito pues bien

a día de hoy en número y forma en número y lugar no tienen justificación suficiente desde el punto de vista de la seguridad operativa que presuntamente

señora consejera una pregunta muy concreta mientras atiende al parlamentario del partido nacionalista vasco

por qué dice esto que usted dice en una radio por qué lo dice en una entrevista telefónica o radiofónica por qué lo expresa de ese modo

para explicarle todo esto porque usted es una irresponsable porque lo que pretende es hacer propaganda porque no le importa solucionar un problema

sino que lo que usted propone y pretende es desprestigiar a la guardia civil porque ese es su único objetivo y por eso en lugar de llamar

este es el asunto por lo tanto responda por qué realiza usted estas declaraciones en una radio en una entrevista por qué no habla con el ministerio porque además resulta que el ministro le propuso en marzo convocar la junta de seguridad

usted se negó a asistir explíquenos por favor esto y es más

acusa a seguridad de crear un permanente estado policial en euskadi al ordenar un mínimo de controles por turno denuncia que usted

del estado para actuar del mismo modo encima a usted le acusan de lo mismo que usted acusa a la guardia civil pero en todo caso señora consejera yo seriedad rigor y responsabilidad usted es consejera de seguridad por lo tanto si usted considera que existe algún tipo de problema hable con el ministro en privado hablen ustedes

pero no haga esto a través de una radio porque canta mucho y evidencia que usted lo que pretende es desprestigiar a la guardia civil ese ha sido su único objetivo

señor maneiro no es mi objetivo

de nadie y no ha sido esa la finalidad y usted lo sabe y le voy a repetir la cifra

en ocasiones con registro de autobuses en ocasiones con largas hileras de coches en algunos casos con

idoneidad y ojalá pudiera decirle que no que todos estos controles están justificados y que no se genera ningún tipo de molestia que son de gran eficacia

que además cumplen con los objetivos y que todo el mundo está encantado de tenerlos pero no le puedo decir eso

si hablamos de los datos de dos mil catorce estamos hablando de once controles por día yo espero que este año por lo menos no tengamos que llegar a estas cifras

estas cuestiones las he planteado tanto al delegado de gobierno como al ministro directamente

le propuso una junta de seguridad una junta de seguridad en la que vetaba hablar de estos temas en la que vetaba

que están estableciendo las fuerzas de seguridad en la que vetaba hablar

esa es la cuestión yo he llamado y he repetido y he planteado estas cuestiones en los foros donde hay que plantearlos

la respuesta ha sido cero

legebiltzarkideok sailburu jauna eguerdi on denoi señor consejero este parlamento ya se ha pronunciado sobre qué quiere hacer con el instituto oncológico que se integre en el sistema público

así lo acordamos hace veinte meses el siete de marzo del dos mil trece

presta un servicio imprescindible al sistema sanitario está financiado básicamente con fondos públicos

no garantizaban ni garantizan el compromiso de sostenimiento del instituto y queríamos salvar el instituto por tanto tal y como dijimos entonces el modelo de concierto sanitario que ha estado en vigor hasta ahora no es suficiente para el sostenimiento del oncológico

la construcción de la sanidad en euskadi en los últimos treinta años ha tenido diferentes hitos un elevado grado de consenso político y social el atrevimiento de un consejero socialista al asumir las competencias

que luego fue imitado por el conjunto de las comunidades autónomas y también supuso la incorporación de diferentes centros hospitalarios

y otras derivando directamente de la iniciativa privada pero como prestaban un servicio público y no tenían garantizada la viabilidad económica se consideró importante la integración en la red pública

así se hizo por ejemplo con el hospital de basurto

por eso no entendimos en su momento y tampoco entendemos ahora por qué no se puede hacer lo mismo con el centro donostiarra por qué el oncológico no puede gozar

a ver no es que haya que recordarle que este gobierno se toma los mandatos parlamentarios a beneficio de inventario como dice un compañero suyo al cajón de los incumplimientos es que aún no hemos encontrado una explicación de

en su momento decía sin ningún dato que lo avale que la integración en la red pública no mejoraría la situación que es como decir que el hospital de basurto o el alto deba no han quedado garantizados con la integración que se hizo en su momento en la red pública es decir lo que usted dice lo siento no tiene fundamento por el contrario

su alternativa de viabilidad para el oncológico pasaba por la planificación de oferta conjunta con el hospital donostia

desde el centro que sí es público es decir el hospital donostia al centro conveniado el oncológico y como complemento y garantía de esta derivación el departamento de salud se incorporaba al consejo de administración del oncológico

propuso en su momento satisfacía a los responsables de la obra social de la kutxa y a los responsables ejecutivos del centro pero es que ahora nos estamos encontrando con otra cosa nos encontramos con que el oncológico va a ser una cosa diferente a la que ustedes nos contaron nos encontramos con que este centro que se sostiene con dinero público al que se derivan pacientes y servicios que deben ser atendidos por el sistema público y al que se le otorga confianza pública

oncológicos va a prestar o alquilar sus servicios a otros servicios no oncológicos nos encontramos con que se ha desvirtuado la función y misión al servicio de los guipuzcoanos para que el centro ofrezca espacio a una empresa privada que va a prestar servicios no oncológicos

que con un centro sostenido con fondos públicos y con un concierto va a ser utilizado por empresas privadas con intereses privados

su departamento de salud que debe velar por los intereses públicos y al servicio público de los ciudadanos ya le hemos dicho en alguna ocasión que es sorprendente

su gobierno mostró un interés inusitado por saber si los ciudadanos estaban dispuestos a pagar de su bolsillo determinados servicios sanitarios hoy gratuitos

que alcancen los ciudadanos por la atención del servicio público pero ahora vamos encontrando sentido a esa curiosidad

que garantiza el derecho a la salud y eso nos preocupa en resumen

de este gobierno va a mezclar intereses privados con interés público

porque esto no podría pasar si hubiera pasado en la red pública si se hubiera incorporado la red pública tal como este parlamento mandató y usted

quiere explicarnos a qué se debe esta decisión qué justificación tiene cuáles son las verdaderas intenciones de este gobierno con un centro privado que ustedes

a pesar de que está sostenido mayoritariamente con los impuestos de los ciudadanos eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi señora roncal como usted sabe y bien a dicho

como obra social en mil novecientos cincuenta y dos además desde hace más de veinte años con los sucesivos gobiernos y no exclusivamente de este partido tiene suscrito un acuerdo de colaboración con el departamento de salud

había hecho una importante inversión con la intención de convertir a onkologikoa en un centro de excelencia para la atención a las personas con cáncer una inversión que implica lógicamente costes estructurales más elevados de los que venía soportando hasta ese momento además esta inversión que realizo el centro a motu propio coincidió con una notable descenso

en los dos años previos al inicio de esta legislatura esta disminución de actividad respondió a cambios importantes en los circuitos asistenciales

por parte de la administración se lo voy a decir más claro el anterior departamento de sanidad se tomó la determinación

obras son amores disminución de la actividad y en consecuencia disminución de la facturación que junto al incremento de los costes estructurales

con muchas incertidumbres ante esta situación y conscientes de la importancia de onkologikoa

y la alta valoración que tiene por la sociedad guipuzcoana porque a nosotros nos preocupa de verdad por eso hemos mantenido el concierto y hemos hecho lo que hemos hecho nos comprometimos

en gipuzkoa una atención oncológica de calidad complementaria universitario donostia y encontramos la clave en la colaboración entre los profesionales de los dos centros para dar una respuesta única y coordinada al paciente oncológico objetivo de las dos instituciones gipuzkoatik ematen den asistentzia onkologikoa eskaintzen jarraitzea

de dotar de estabilidad económica a onkologikoa como excusa para no cumplir una proposición no de ley probablemente incumplible

pues mire nosotros no compartimos esa opinión y yo estoy casi seguro de que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas tampoco

además de iniciar un proceso de integración funcional lo califica usted en el escrito de petición de la interpelación de excusa una excusa para qué

ginean onkologikoa es propiedad de la obra social de la kutxa

es además el buque insignia de su obra social y al menos este consejero

quiera desprenderse de él tampoco he visto yo nunca que un banco o una caja

que un bolígrafo o un calendario de mano otro de los motivos por los que no consideramos la opción que plantea es el de que estamos convencidos

muchas legislaturas es una buena base sobre la que construir un proyecto de integración funcional en clave de colaboración entre instituciones servicios y profesionales en cuanto a los proyectos de onkologikoa

usted los conoce los expuso su directora gerente en la comisión de salud el cinco de junio del dos mil trece expuso su preocupación

en consolidar el papel del centro en el servicio sanitario público como elemento nuclear de su estrategia también expuso ante la comisión

mantener la captación de pacientes externos procedentes de compañías de seguros y mutuas porque esto suponía el quince por ciento de los ingresos del centro y lo he sacado

con el componente concertado de la actividad del centro estaría bueno que cuando una institución privada se organiza para funcionar y dar servicio a la administración pública nos pareciera mal

o fuera una actividad incompatible con el concierto pero no creo que es el caso pero bueno retomando el trabajo conjunto

y los objetivos planteados estos meses le transmitiré que

y la radiofísica de gipuzkoa habiendo atendido ya más de quinientos pacientes con muy buenos tiempos de respuesta los profesionales de ambos centros

ha supuesto mejoras importantes en la coordinación de la atención se ha conseguido la coordinación de equipos de ambos centros y la participación conjunta en comités de tumores se ha consolidado la actividad de onkologikoa

en la atención oncológica se ha conseguido la normalidad en la actividad asistencial

la estabilidad mediante la dotación de una financiación ajustada a la actividad concertada y lo que es más importante se ha conseguido una atención oncológica

aprovechando el conocimiento científico de los profesionales y la tecnología de ambas instituciones hemos dotado a la relación entre el departamento de salud

que firmamos el pasado diecinueve de diciembre dotando al centro de la estabilidad económica que necesitaba y poder avanzar en los procesos de integración

adquirimos el compromiso con onkologikoa con sus trabajadoras y trabajadores con la sociedad de gipuzkoa y con la atención oncológica en general este es el camino iniciado

hacia un modelo de atención que entendemos está dando frutos en el presente y que tiene perspectiva de futuro

sí gracias presidenta señor consejero si quiere hablamos de la situación de la sanidad en gipuzkoa mire usted la policlínica la clínica del pilar y otros centros privados están cerrando o necesitando fusionarse con grandes empresas para sus sostenibilidad y ahora hablemos

en algunos casos disminuyen las derivaciones como en estas empresas que cierran o se tienen que fusionar y en el otro aumentan hablemos de por qué sus soluciones con respuestas privadas con su propio riesgo y ventura

y otras desde la fortaleza del apoyo público aprovechan para hacer negocio añadido ampliando su oferta privada y diferente a la oncológica

no era eso lo que nos aseguró usted que satisfacía también a los responsables del onkologikoa

nos anunció como alternativa a la integración esa planificación conjunta con el donosti para la atención monográfica de los problemas oncológicos y así ofertado y aceptado por los guipuzcoanos es que sus argumentos no eran ciertos o es que ha pensado ampliar el concierto a estos nuevos servicios del onkologikoa garantizando un flujo de pacientes

señor consejero todo indica que la nueva empresa privada que va a utilizar este centro sostenido con dinero público va a ser el igualatorio médico quirúrgico sin duda una gran empresa sanitaria reconocida por muchos ciudadanos que lo sufragan de forma particular para lograr servicios o atenciones

antes de ser consejero y que su departamento a través de su viceconsejero

que avala esta decisión lo menos que necesitamos saber de usted es si ha participado directa o indirectamente en la determinación de que esto pueda ocurrir necesitamos que aclare qué garantía de trabajo y beneficio

porque en todo esto puede quedar una sospecha fundada de que usted es el garante del igualatorio de que está usted al servicio de lo público para gestionar lo privado una sanidad privada a la que usted está dedicando mucho tiempo y desvelos y que afecta al sistema público

y con el código ético que suponemos usted firmó tiene que aclararlo porque ya le advierto que si de este pleno salimos con dudas seguiremos tomando las iniciativas correspondientes

ni por aproximación lo que ocurrió con el último consejero nacionalista de sanidad

como ocurrió con aquella privatización de las listas de espera despeje dudas y en dos semanas en este parlamento debatiremos la moción que ya le anuncio

de su función y misión oncológica y para impedir

en clara competencia desleal con el resto de empresas privadas

parece orientarse ahora hacia el sector privado en un cambio de vocación del centro y me piden que dado que participamos en estas decisiones en el patronato de onkologikoa les informe acerca de la intención del departamento pues muy bien señora roncal

conoce o debiera conocer está formado por diez personas ocho miembros de pleno derecho y dos invitados los miembros de pleno derecho se distribuyen de la siguiente manera un representante de kutxabank un representante de la fundación de kutxabank

dos representantes del colegio médico de gipuzkoa un representante del departamento de salud

hemos entrado en esta legislatura un representante de eh bildu y un representante de su partido el partido socialista que está allí desde bastante antes que nosotros afirma que el departamento de salud que cuenta con un miembro en esta junta debemos de haber tomado parte en esta decisión a ver señora roncal mire ha participado en esta decisión el representante del partido socialista si es así también me gustaría saberlo porque yo ya le aseguro mire el representante el representante del departamento de salud

si ha hablado usted con el representante de su grupo político sabrá que la decisión de diversificar la actividad no es algo que haya sido tratado ni discutido en el seno del patronado

a las que informarán del contenido y de las decisiones que se adoptan en el seno del patronato como usted sabrá

no tiene ningún representante en el mismo ninguno de todas formas mire nosotros no tenemos nada que decir a este respecto

complete sus ingresos con otras actividades complementarias

no atendían antes pacientes privados y de compañías aseguradoras

o cerrado la verdad es que el descenso de las derivaciones de la pasada legislatura fue voluntario y muy significativo me preguntan acerca de la intención

nuestra voluntad es la de mantener el compromiso de estabilidad a través del concierto apostamos por seguir trabajando por consolidar una atención oncológica integrada y de calidad queremos en ofrecer conjuntamente la atención oncológica posible y queremos también que este hecho pasa por el proceso de integración que hemos iniciado

de información único y otros aspectos que pueden favorecer la cooperación científica

señora roncal pregúntese quién es el responsable de la etapa de mayor incertidumbre

y pregúntese también quién es el responsable de que actualmente vuelva a ser un centro estable e inmerso en un proceso de integración funcional

por mi parte yo no vengo aquí a responder del igualatorio médico quirúrgico al que a día de hoy ninguna relación es la segunda vez que hace usted esa referencia y miente

miente pregunte usted cuándo quiera las cifras de facturación de esta legislatura y de la anterior

la cifra de conciertos y no engañe al ciudadano sail honek behin eta berriro zabaldu du

gracias presidenta en los dos últimos meses el partido nacionalista vasco ha metido la quinta marcha

en el congreso de los diputados queriendo acorralar a la ministra de fomento y al gobierno de españa cuestionando fundamentalmente los compromisos del gobierno central la palabra de la ministra a la que acusa de mentir la credibilidad de su ministerio y así

para hacer oposición pero poco conciliadores si queremos abonar un clima propicio para el entendimiento y colaboración interinstitucional que requiere el proyecto del tren de alta velocidad tanta beligerancia

con la escasa autocrítica y la gran comprensión que el partido nacionalista vasco profesa con el gobierno que sustenta el gobierno de aquí

y retrasos son atribuibles al gobierno vasco el retraso inesperado del ramal guipuzcoano del tren de alta velocidad por parte del gobierno vasco

así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos por eso le solicito que me responda a la siguiente pregunta que

y además me dice que el retraso inesperado del ramal guipuzcoano las obras que está llevando el gobierno vasco

efectivamente estamos haciendo por encomienda de gestión se están desarrollando a buen ritmo y con

tema concreto que hemos podido tratar también en la comisión insisto son obras que siguen a buen ritmo y que en cualquier caso no comprometen de ninguna manera el ritmo de su ejecución no compromete de ninguna manera que

por lo que se refiere al tramo que está gestionando el gobierno vasco eso sí astigarraga oiartzun lezo tartea eraikitzeko proiektuak

azpiegituretako idazkari nagusiari por tanto las

o no certezas determinación para el año dos mil veinte es la cifra por la que usted me pregunta

bajo nuestra encomienda sino de las que tiene todavía pendientes el ministerio de fomento eskerrik asko oregi andrea ruiz andrea zurea da hitza

se han retrasado dos años las fechas comprometidas oficialmente y aquí no pasa nada los vascos y la oposición tenemos que ser comprensivos como no faltaría más

cómo no ver la viga en el ojo ajeno pero tampoco la viga en el propio

refiriéndose al ministerio de fomento que tienen que aplicarse más que hay que acelerar el ritmo que hay que pasar de la teoría a los hechos bien lo que es un hecho es que su gobierno lleva un retraso de dos años en el final del ramal guipuzcoano

si va a haber más imprevistos si va a haber más retrasos pídanos la comprensión que al menos sus representantes en el congreso van a tener con el ministerio ni más ni menos porque también es un hecho que en los tres años que llevamos de legislatura en el gobierno de españa se han destinado dos mil doscientos cincuenta millónes de euros un ochenta y tres por ciento más

ocho años anteriores y que la ministra ha garantizado continuar con el ritmo inversor

para españa y para europa seamos serios y ecuánimes y apliquémonos todos y pida a sus diputados que no sobreactúen en madrid como no sea que quieran que hagamos lo propio

que es donde aquí hay que controlarles a ustedes a su gobierno y a sus incumplimientos gracias eskerrik asko ruiz andrea oregi andrea zurea da hitza

la información relativa a los contratos de los diecisiete tramos entre bergara y astigarraga está a disposición de esta cámara y figura en la misma los costes relativos a los proyectos modificados los complementarios los expedientes de emergencia las revisiones de precios las repercusiones de variaciones de iva todas las incidencias que han ido pasando y las que irán pasando las iremos reflejando y se las iremos enviando

en esta cámara trimestralmente enviamos como usted sabe el informe y ahí están

y está establecida toda la planificación que el gobierno vasco y mi departamento tienen para el tramo que nos compete

y las incidencias se van recogiendo y se van poniendo ahí para que estén perfectamente visibles ahora bien

pues no lo voy a hacer voy a seguir exigiendo al ministerio que cumpla sus compromisos porque no son solamente compromisos del gobierno de españa son compromisos del gobierno de españa son compromisos de la unión europea

son cuestiones clave establecidas en la planificación de transportes europea y por tanto creo que

dos cosas le pido al ministerio dos cosas y las voy repitiendo ya muchísimas veces una planificación completa de todo

con qué estamos haciendo las obras con qué parámetros con qué parámetros temporales económicos etcétera

y dos ese compromiso el compromiso ha existido en sede en el congreso y en el senado por parte del señor rajoy y por parte de la señora ana pastor de los dos

incumplieron sistemáticamente lo que pedimos es la planificación completa y el cumplimiento de los compromisos nada más que eso si usted me quiere exigir

cuatro y cinco no son prioritarias la duda de los vecinos de rekalde

las líneas la duda es si son algo o si van a ser algo algún día

en la comisión de presupuestos sea mayor que la de los vecinos de rekalde y no porque una infraestructura sea menos necesaria que la otra sino por que los bilbaínos de rekalde están más mentalizados digamos que han tirado más la toalla por desgracia están más mentalizados de que el pnv

en cualquier caso aunque usted ha apelado a motivos económicos y prioridades presupuestarias creo

que es más que razonable que vecinos y oposición nos preguntemos si ustedes renuncian definitivamente a ambos proyectos mi pregunta señora consejera va en ese sentido y por ello le pido que me aclare que nos aclare que aclare a los vecinos

y o políticos los que determinan la renuncia del gobierno vasco a los proyectos de las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao gracias eskerrik asko

expliqué en comisión expliqué en la comisión no hice ningunas declaraciones expliqué en la comisión

del año dos mil quince cuáles eran las prioridades de nuestro departamento en lo que

a las cuestiones de transportes y también de medio ambiente y efectivamente en esa comparecencia expliqué que en las prioridades o en el nivel de priorización que habíamos hecho no nos encajaba para el año dos mil quince creo que añadí ni dos mil dieciséis por tal y como tenemos los créditos de compromiso

las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao en este momento estamos como usted sabe haciendo la línea tres haciendo los trabajos de construcción de la línea tres

a la vez y estamos haciendo un esfuerzo inversor de cara al dos mil quince y también dos mil dieciséis en esa línea además también tenemos en la línea uno en urduliz

las obras para quitar el paso a nivel en esa zona y que creemos que también es

por irme solamente a prioridades en la materia de transporte sin entrar materias de mi

también hace poco se ha puesto en marcha la línea dos con la estación nueva de cabieces y estas son las prioridades presupuestarias

y a ese tipo de obras respecto a la línea cinco estamos llevando acabo trámites ambientales y estamos trabajando también en el proyecto que se formulará una vez que se formule la declaración de impacto ambiental seguimos trabajando en esos proyectos porque creemos que son proyectos a futuro

vecinos de los barrios afectados porque cómo cambia el cuento hace cuatro años por ejemplo el debate estaba

a mí me gustaría señora consejera que su respuesta de hoy no generara más falsas expectativas a los vecinos

creo que no son tolerables más incertidumbres y usted me dice sí es que vamos a trabajar a futuro pero

pero sí que le pediría que no se quitara hoy la preocupación del medio para que los vecinos siguieran generándose expectativas a nuestro grupo

que a un aplazamiento por motivos presupuestarios

hoy aprovechar la ocasión para reconocer o para sacarme a mí de dudas y eso realmente es una renuncia oficial y definitiva

han sido muchos años de expectativas de espejismos

estas dos líneas de metro con proyectos informes infografías noticias anuncios

entre el partido nacionalista vasco cuando estaba en la oposición y el partido socialista

en donde no les importó instrumentalizar a los vecinos con tal de meterse

y yo lo que pido es que dejen claro a los vecinos de qué tiempo estamos hablando de si renuncian o no a estos proyectos si va a haber algún día pero no en el horizonte lejanísimo si algún día van a tener metro en bilbao

pueden contar también con metro a su barrio que les acerque a la capital y al hospital muchas gracias eskerrik asko ruiz andrea amaitzeko oregi andrea zurea da hitza

estamos en un escenario que nos está obligando a una priorización muy rigurosa y

por todos los ámbitos pero que es absolutamente responsable con lo que tenemos encima de la mesa y con la capacidad presupuestaria que tenemos lo que no vamos a hacer es embarcarnos en cuestiones que no podemos pagar eso esta claro por tanto por las

con los plurianuales que arrastramos con esas obras y con las priorizaciones que hemos establecido y que son las que expliqué en la comisión en la presentación de presupuestos

veo posibilidad de iniciar las obras de la línea cuatro y cinco

ahora bien no renunciamos a ellas y seguimos trabajando

en relación a la línea cuatro el estudio informativo y en relación a la línea cinco toda la tramitación ambiental y la definición de los parámetros

a partir de esa perceptiva declaración del impacto ambiental eskerrik asko

gasteiz dos mil catorceeko azaroaren hogeita zortzian